en estos últimos años estamos asistiendo a una erosión planificada del sistema educativo en su conjunto la regresión que ha supuesto

algún tiempo y los serios recortes que se vienen aplicando a becas investigación educación superior nos ratifica una vez más en la convicción de la que la educación

un bien público del que dependa fundamentalmente el progreso de un país en igualdad de oportunidades para todas las personas sino más bien una mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda

para quienes puedan pagarla el real decreto catorce barra dos mil doce que originó la mayor subida de tasas de la democracia fue enfrentado en esta comunidad lo dejamos sin consecuencia no lo aplicamos por el gobierno

fueron devastadoras en algunas comunidades

en las que llegaron a subir hasta un sesenta y cinco por ciento impidiendo el acceso a la universidad de familias de escasos recursos económicos y que sufren más en un tiempo de crisis y de desempleo como en el que nos encontramos baste

hace apenas unos meses la señora gomendio segunda autoridad del ministerio de educación del país grande

no es sostenible es una ecuación imposible añadió el hecho de que en españa se tenga una de las mayores tasas de acceso a la universidad

y unos sistemas de precios más bajos el problema es que la educación no es gratuita y la pregunta es quién lo paga cuándo y cómo estas declaraciones que vienen a ser secuencia de algunas otras como en este país hay muchas universidades hay demasiados universitarios o hay demasiados investigadores que llegó a afirmar la

realmente forman parte de una secuencia que cualquier ciudadano del país

si lo dijera pero que en un responsable político del ministerio de educación no solo resulta inaceptable sino que además suponen un claro atentado a lo que significa el aprovechamiento del talento colectivo que

también esta incoherencia dicha por

tiene consecuencias como las de que el gasto público en educación superior haya descendido

al cero coma ochenta y tres en dos mil catorce aun con un pib menor cuando

está situada un poco más abajo que el uno coma cinco en educación superior así que lo que viene a decir la señora gomendio

que la educación es tan cara que no es sostenible y uno ha de preguntarse sostenible en relación a qué cómo hablar de educación de educación superior en este caso en términos de precio cómo puede atreverse a hacer semejante afirmación

de aquel refrán inglés lo voy a decir en castellano ya sé que ustedes todos entienden inglés pero no importa

en inglés me dicen if you think education is expensive try ignorance

este es justamente el tema si usted cree que la educación es cara

miren ustedes cuando parecía que ya

apenas el soplo de una vela para que este ministerio hiciera mutis por el foro aparece con una nueva medida dictando un real decreto el de dos mil quince para reformar la estructura de los grados y no crean ustedes que esta es una traca semifinal que aparece por sorpresa es una medida

por el ministerio de educación español y que atiende a dos objetivos

al objetivo de déficit público a poder ser cargándolo en muy buena medida a las espaldas de la educación

resituar es decir rasear la oferta de educación pública

una oportunidad a las universidades privadas de esto que les estoy contando da buena cuenta es decir no es una especulación está afirmada por los datos da buena cuenta el hecho

el compromiso de control de déficit para el periodo dos mil doce dos mil diecisiete que presenta el gobierno de españa a bruselas en él se establece un ajuste en la enseñanza universitaria de nada menos que

y esta medida viene a salir al paso de esos tantos restantes por tanto señorías no podemos de ninguna de las maneras aceptar que tras haber hecho una reforma

estructural que parte de un país que tenía licenciaturas de cinco años y que estructura con una gama

aquí hago un paréntesis no debemos compararnos con alemania porque alemania entre otras cuestiones tiene un año más de bachillerato

cuando la inmensa mayoría de las universidades están evaluando sus títulos para acreditarse cuando todavía todo este proceso está coexistiendo con el final de las licenciaturas de cinco años hete aquí que el señor se atreve a abrir otro proceso para que si entre comillas discrecionalmente de manera dispositiva

en esta ocasión sí de su capa un sayo y puedan instaurar titulaciones de tres títulos de grado de tres años

con lo que se hace una reforma estructural muy muy de fondo que afecta no solamente a la cantidad de alumnos que hay en el sistema sino obviamente y consecuentemente a la cantidad de profesorado que hay en las universidades a las devaluaciones de los títulos puesto que oiga usted puede llegar al mismo título unas veces con cuatro años y otras veces con tres y además usted tendrá

cantidad de educación lo que es menos calidad de educación menos empleabilidad y se dará una oportunidad a las universidades privadas y ustedes dirán por qué ya me está diciendo el señor oyarzabal con la cabeza que eso no lo va a aceptar

una idea clara de por qué porque las universidades privadas

alumnos proporcionalmente de máster que de grado proporcionalmente por lo tanto les están dando una oportunidad a las universidades privadas

así que nosotros no vamos a aceptar queremos que esto se retire queremos que se derogue queremos que retire este real decreto desde luego un real decreto que suscitó la alarma no solamente del consejo de estado sino también

que pidieron inmediatamente una moratoria por lo menos hasta el año dos mil diecisiete para evaluar y presentar una nueva propuesta y

real decreto que rompe de alguna manera la estabilidad de las enseñanzas universitarias y la calidad de la oferta con

debe ser retirado debe ser retirado porque no queremos que ninguna de las universidades del país acometa

esa nueva ordenación por eso hemos podido llegar a una transacción entre el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialista que yo

el apoyo de los restantes grupos que lo que viene a hacer es solidarizarse y además respaldar

en el sentido de que no se puede implantar ni siquiera de manera dispositiva ese real decreto que produce un extraordinario desorden y devalúa

para que el parlamento vasco igual que hiciera ya en su reunión del veinticuatro de julio del año pasado en la conferencia general de política universitaria el gobierno vasco pidiera la retirada de este real decreto y para solicitar un informe tanto

al consejo de universidades como al consejo de estudiantes para que elaboren de alguna forma un informe sobre qué impacto

están teniendo las enseñanzas de grado qué impacto tendrían en términos económicos y en términos de calidad

suscitan y como podríamos hacer una nueva

planteamiento acordado con diagnóstico y desde luego con tiempo para esto hemos llegado a un acuerdo y yo espero que el resto de la cámara

azaldutakoak dira eta errepikatu egingo ditut eta zaldu egingo ditut decía que las razones que han provocado el rechazo de las medidas tomadas por el ministerio fueron ya esgrimidas en su día por la representación del departamento de educación en la citada conferencia general de política universitaria en primer lugar

como está ocurriendo en europa con grados de tres años el sistema será más débil si se generaliza los grados de tres años

se traslada en bloque al máster obligando al alumno que quiera desempeñar plenamente su profesión

dichos estudios de máster la necesidad de cursar un máster lejos de permitir

aumenta el tiempo de permanencia del alumnado en el sistema quebrando encareciendo

del acceso a la enseñanza universitaria lo que se consigue con esto por lo tanto es alargar y encarecer la profesionalización las asignaturas básicas no profesionalizantes se quedan en el grado y las asignaturas que permiten acceder al mercado laboral de especialización

alargar y encarecimiento del sistema es lo único que se consigue en segundo lugar se dijo que la convivencia de grados de diferentes estructuras y duraciones dificultará la orientación del futuro alumnado y creará una situación

a la premura de su implantación no permitirá desarrollar títulos sin que exista una devaluación de la formación en lugar de conseguir la homologación con europa

más opaco en una universidad un grado puede ser de tres años y en otra el mismo grado ser de cuatro años como ya han dicho compañeros que han intervenido anteriormente con esto lo que se consigue es que el sistema homologable con europa para la administración es muy difícil valorar los grados

no puede valer lo mismo ni académicamente ni económicamente un grado de tres que de cuatro años el decreto por lo tanto

ya que no mejora la inserción laboral ni consigue promover la movilidad internacional con un sistema más transparente y homologado al espacio

estudiar en nuestro sistema como para el alumno vasco que quiera completar sus estudios fuera la variabilidad en la estructura de las titulaciones dificultará enormemente el sistema de equivalencias y homologaciones haciendo mucho más opaco el sistema

que la reforma era extemporánea ya que se está proponiendo una reforma sin haber evaluado aún el resultado de los grados de cuatro años

actuales por parte del alumnado y de los empleadores nos avoca de nuevo inevitablemente a una reforma arbitraria y carente de criterios y evidencias

sí que votaré a través de la transaccional que han firmado

de esa transacción decía el señor isasi que la señora celaá

pues yo creo que no porque efectivamente los argumentos de la señora celaá ya han sido discutidos han sido rebatidos y han sido desmentidos ya en la carrera de san jerónimo en varias ocasiones

le voy a tratar de explicar cuál es el contenido real del decreto porque laseñora celaá no ha venido a contarnos aquí de qué va el decreto no se ha metido en profundidades ha hablado de qué dijo la señora gomendio

que si el gasto que si al pp no le gusta la educación y menos la universidad

esas cosas pero no ha entrado en lo que nos ha traído aquí que es el decreto y no ha sostenido con ningún tipo de argumento pues las supuestas consecuencias que dice que nos trae este decreto yocreo que tenemos que contrarrestar explicando exactamente de que se trata la fantasía o la tergiversación que se ha intentado dibujar

grupos políticos y analizar las consecuencias yo creo que vamos a tratar de hacerlo de manera rigurosa señora corrales

en los países con los que nos tenemos que comparar en la unión europea

con los países de la unión europea el euro con esos ya le voy a decir

mire el proceso de adaptación de los sistemas de educación superior a bolonia la mayor parte de los países y lo demás es mentira la mayor parte de los países adoptaron un sistema flexible que es el que ahora plantea el gobierno del partido popular un sistema flexible mediante el cual

pueden tener entre ciento ochenta y doscientos cuarenta créditos o sea entre tres años y cuatro años a decidir por las universidades de manera voluntaria

y los créditos y las de máster entre sesenta y ciento veinte créditos uno o dos años de máster

uno ó dos años de grado uno o dos años de máster todos los países decidieron eso ese era el modelo flexible y que fuesen las universidades

en el ejercicio de su autonomía quienes pudiesen decidir hacia qué modelo iban por tanto la mayoría de los países europeos conviven con esos grados de tres o cuatro años y con el máster de unos años por el contrario españa esto que dicen ahora es que el gobierno ahora se precipita no españa se precipitó

según el cual los grados tenían que tener solo doscientos cuarenta créditos

o sea en españa se decidió que por decreto

y a correr rigidez rigidez y absolutamente eso si que era una imposición a las universidades contra el criterio que quienes pedían entonces la flexibilidad oiga la crue

los rectores este país necesita muchas reformas reformar la política la administración también la universidad y la casta universitaria mire lo que decían los de la crue en el año dos mil seis es que es muy importante

hoy y ayer hoy y ayer por qué sabe por qué señora celaá le iba a tratar de tú porque casi todos son los mismos mire lo que decían podría optarse decían entonces

tener todos los grados de cuatro años y máster de un año decían los rectores entonces podría optarse por

en la que existieran grados de entre ciento ochenta y doscientos cuarenta créditos no está claro que todos los grados necesiten ni deban tener una misma carga de créditos podemos hacer lo que están haciendo otros países de nuestro entorno oiga

que el modelo flexible que ellos pedían en el dos mil seis ahora no les parece adecuado les parece un poco como

y vamos dos años compartiendo con universidades públicas privadas con representantes del sector y además sobre todo tratando

de lo que está pasando el sistema cuatro más uno escogido por españa es una rareza en el ámbito europeo señora celaá señora corrales señor isasi está a otra historia es para que nos traiga las competencias aquí entonces y luego ya veremos

esto es otra historia pero el sistema cuatro más uno en europa lo tienen

chipre turquía o sea el que ustedes defienden ya solo lo mantienen chipre turquía armenia georgia grecia kazajistán

con el planteamiento que está haciendo nuestro gobierno quién dice que nos aleja de europa

nosotros queremos estar en la centralidad de europa pero a qué esquina de europa nos quieren llevar ustedes

nosotros estamos defendiendo lo que están en este momento poniendo y además ya con resultados encima de la mesa los países con los que nos tenemos que comparar en europa por otra parte se solucionará por supuesto todo el problema del estudiante español que quiera acceder a sus estudios

a inglaterra a italia a alemania dice la señora celaá que no nos comparemos con alemania no

con kazajistán pero nuestros estudiantes cuando quieren salir fuera pues prefieren hacerlo a estos países

les vamos a facilitar mucho las cosas a aquellos que quieran hacer estudios de postgrado

en la europa desde luego en la que nosotros creemos y la europa en los países que van a ser y que están siendo motor de europa también en los resultados educativos

si quieren realizar estudios de doctorado en las universidades extranjeras o sea se ven abocados a estudios complementarios si quieren realizar másters allí

la estrategia de internacionalización exige que vayamos por este camino la titulación universitaria de grado es la que permite el acceso a la vida profesional señores no se rebajan los niveles de formación de la población universitaria ni se obligará a los alumnos

serán las universidades las que van a decidir qué grados

y además el treinta por ciento de las titulaciones medicina las ingenierías todas aquellas titulaciones

esas titulaciones se van a mantener con los créditos que tienen hasta ahora

no se reducen a tres años las titulaciones ingenierías medicina las titulaciones estas no se reducen no entran dentro del decreto están fuera

están en este momento teniendo por delante la oportunidad de que en las titulaciones nuevas en aquellas titulaciones donde tenerle al alumno cuatro años en la universidad lo único que hace es retrasarle su incorporación al mercado laboral estamos

sus oportunidades se respeta la autonomía universitaria como decía porque esto

que han dicho que esto se tenía que hacer ya que vamos con retraso que estamos a la cola de europa porque ustedes los socialistas se empeñaron en hacer esto eso sí en el dos mil seis deprisa y corriendo y tratando de parecerse a kazajistán y a otros países de por allí se trata de flexibilizar la oferta universitaria de establecer horquillas

créditos las universidades podrán establecer combinaciones grado másters más idóneas para cada título y habrá títulos

necesariamente la entrada en el mercado laboral y el acceso a la empleabilidad será directo con el título de grado y habrá otras titulaciones en las que las universidades entenderán que necesitan un máster de un año o habrá otras incluso que las universidades ofertarán las universidades públicas también ofertarán

señorías se tienen que poner las pilas también en los cursos de postgrado tienen que saber competir

y este sistema que me decía el señor isasi el otro día que afecta a la universidad vasca y a todas las universidades españolas

generado esta endogamia en la que son los mismos los que se eligen a los profesores y dentro de los mismos grupitos van generando ahí

de eso sí que saben algunos de los que hablan por ahí de castas bueno pues vamos a ver si las universidades públicas también con esta capacidad que van a tener de competir

yo creo que van a permitir en este momento mayor movilidad mayor internacionalización y en este caso yo creo que también una mayor

que más acordes también con el mercado laboral y a partir del segundo turno señora presidenta yo creo que voy a explicar que todo esto no tendría sentido si el principal objetivo que nos tiene que llevar a tratar de reformar y de mejorar nuestro sistema universitario es el de buscar una mayor empleabilidad de los jóvenes y ya les voy a dar los datos porque no sé en kazajistán cómo andarán

en la empleabilidad de nuestros universitarios si nos comparamos con italia con alemania con francia y con inglaterra no sé si nos comparamos con kazajistán como esta vez pero le voy a dar los datos

pues señor oyarzabal esperaremos a la réplica para quedarnos pegados porque realmente realmente mire que le he advertido no nos compare con alemania

y con alemania no queremos compararnos en educación entre otras razones porque a los once años

y entre otras razones porque el bachillerato en alemania dura un año más con lo cual los créditos

ciento ochenta o pueden ser de ciento ochenta créditos una cuestión completamente diferente a la de la enseñanza española como usted debería y sabe además conocer por tanto

ustedes consideran que la educación es una mercancía y este es el problema

consideran que es una mercancía y por lo tanto más vale que la mercancía sea low cost hay demasiados universitarios en este país hay demasiados investigadores en este país

reales decretos vamos a dictar un real decreto para que hay menos universidades decía wert hay diez universidades en california no mire usted en california

lo que viene a hacer para que no me diga que le estoy hablando de la abuela que fuma

de los títulos naturalmente no se mete con aquellos títulos que son conducentes a profesiones

arquitectura ingeniería y medicina no claro a estos hay que salvaguardarlos alguien tiene que liderar el país oiga

de amos y de criados y eso ni hablar eso ni hablar por lo tanto mire usted los créditos cada crédito cuesta

sabe cuánto cuesta cada crédito en máster entre veintiséis y cuarenta euros sabe usted en qué proporción están los estudiantes de grado en las universidades privadas pues en un catorce por ciento sabe usted

en un veintisiete por ciento y las universidades privadas quieren apuntarse inmediatamente a los títulos de grado

mire usted esto es una barbaridad una barbaridad que una vez más llega sin diagnóstico

ya bastante difícil es cuadrar el sistema como para moverse sin diagnóstico si ahí no hay diagnóstico no puede haber diálogo y si no hay diálogo no puede haber consenso

que se hace de los títulos de grado en el proceso bolonia en españa es coherente

de cuatro años de otros lugares europeos la mayoría oiga no nos compare con kazajstán o como usted le quiera llamar que no sé si es así o si es de otra manera

curiosamente nuestro modelo nunca ha sido alemania el suyo sí el nuestro ha sido finlandia en educación finlandia y otros países

en la que ustedes tendrán rectores imagino imagino que la crue no estará llena de rectores del psoe

pero desde luego de todas maneras si estuviera encantados eso quiere decir dónde está la inteligencia

en consecuencia está en la izquierda está en la izquierda está en la social democracia está en la izquierda en consecuencia que toda la conferencia de rectores llegue a manifestar la necesidad de una moratoria

indicará al menos que después de haber reorganizado su casa de una determinada manera con doscientos cuarenta créditos cada título cuando todavía se están implantando y están consistiendo con licenciaturas de cinco años cuando está todo este remolino ustedes se les ocurre de la noche a la mañana lanzar encima de la mesa una nueva reforma estructural

vamos a evaluar a ver lo que está pasando a lo mejor necesitamos un año más en el bachillerato por cierto la propuesta que hizo elseñor wert en la primera conferencia sectorial

no me diga que sí no me diga que sí porque enseguida la retiró

el futuro pasa por esto y el pasado pasa por lo otro ya vienen tardando

tres telediarios ya vienen ustedes tardando para implantarlo cuando resulta ser tan importante tan moderno tan contemporáneo y tan igualitario sabía usted le voy a dar un último dato y me voy a mi sitio solo una cosa

también comprobable también verificable sabía usted qué probabilidades hay para los hijos de los trabajadores de estar

qué probabilidades tiene el hijo de clase media o alta

setenta y cinco por ciento hoy datos del cis

no están haciendo mucho por la igualdad y desde luego la propuesta que ustedes traen en ese real decreto por cierto

de este mismo año por lo tanto estamos en tiempo por mucho que se haya debatido en la carrera de san jerónimo amaitu mesedez

es favorable a la desigualdad y nosotros eso
no lo podemos tolerar porque la educación es el futuro de los pueblos nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea eh bildu taldearen ordezkaria isasi jauna zurea da hitza

por un lado tenemos a la señora celaá que nos dice que no debemos de compararnos con alemania porque los sistemas educativos son diferentes y bueno le puedo dar la razón y por el otro lado tenemos al señor oyarzabal que nos dice que sí debemos compararnos porque alemania

debe de ser usted realista porque alemania sí es cierto que país referente en materia universitaria está viendo que con tres años no se prepara lo suficiente al alumnado

por lo tanto tomemos también esos datos de referencia para saber qué es lo que hay que aplicar en españa o no hay que aplicar como ya dijo el gobierno vasco en su día esta reforma es una ocurrencia y una improvisación al igual que he dicho en mi primera

se cambia por cambiar sin haber evaluado el sistema anterior y sin orientación alguna se puede creer que en algún sistema del mundo

pues ni económicamente ni académicamente pueden ser nunca iguales esta reforma de verdad que nos preocupa seriamente al ministerio

igualdad de oportunidades ni la equidad con esta reforma vuelve

y en la inequidad ya lo hizo cuando quitó la beca a muchos alumnos que tenían nota para entrar en la universidad en este caso y ahora profundiza en la exclusión al volver rechazar del sistema a aquellos que no pueden pagarse el máster con esta reforma como he dicho y como ya hemos repetido unos cuantos intervinientes se alarga y se encarece la profesionalización se consigue un sistema menos transparente señor oyarzabal más opaco en una universidad un grado puede ser de tres años y en otra de cuatro años el mismo grado en lugar de conseguirse una homologación se vuelve el sistema más opaco para finalizar

posición que en su día adoptó en solitario el gobierno vasco y por todo ello solicitamos el apoyo a la transacción

a contestar desde luego creo señora celaá que usted no está pensando en los alumnos cuando sale aquí a hablar no piensa en los alumnos no piensa en los universitarios usted está pensando en los rectores

en las estructuras en los de los sillones los choferes y todas esas cosas nosotros

y las oportunidades de los alumnos ahora claro hay quien no quiere hay quien se resiste y luego hay algunos que considera que esto es bueno pero si lo hacen ellos si lo hace el pp no

del partido socialista de andalucía respaldó este acuerdo en la conferencia sectorial de política universitaria luego fue desmentido por la señora susana díaz fue desmentido

cuatro universidades catalanas ya han anunciado que van a ser seguramente las primeras en el dos mil dieciséis en programar grados ya los están anunciando de tres años mire

sí que tengo algunos datos para darles y no son de alemania porque a ustedes alemania no les gusta nada oiga quién les iba a decir a los del pnv que ahora desde luego alemania no les gusta nada que prefieren ellos compararse

kazajistán mire si ustedes dirigiesen un país como dios manda estarían ustedes ya

como han hecho todos los países de nuestro entorno pero ustedes están simplemente a rebufo de lo que otros hacen en madrid

de empleabilidad que es a lo que venía y mire la empleabilidad

si comparamos la empleabilidad que tienen los jóvenes que alcanzan el grado en españa en este momento último dato del eurostat cincuenta y nueve coma nueve por ciento

los que alcanzan ese grado en el sistema inglés por ejemplo vamos a olvidarnos de alemania vamos a sacar aquí a inglaterra les gusta más inglaterra pues mire si lo comparamos con el inglés

como el alemán hasta con el italiano lo podemos comparar estamos en una situación muy desfavorable la media europea señorías la media de empleabilidad

en el cincuenta y nueve pero no nos vamos a fijar

no vayan a ser los más listos vamos a fijarnos en inglaterra pues en inglaterra están en el ochenta y dos por ciento y nosotros en el cincuenta y nueve oiga no nos podemos empezar a parecer un poco más

en estas cosas porque los alumnos que no están pensando en la comodidad de los rectores

sus títulos sirvan para algo aquí y en europa no que sean papel mojado

mantener a no sé qué plantillas quieren títulos que sirvan aquí y fuera de aquí quieren másteres que desde la pública sirvan aquí y fuera de aquí y que compitan con los másteres

de la pública quieren mejores oportunidades para poder competir mejor

aquí y fuera de aquí pero no con los de kazajistán ni con los de armenia quieren competir con mejores oportunidades

y la equidad porque dice usted que la introducción de todo esto de grado de tres años supone un ataque a la igualdad de oportunidades y es todo lo contrario

es que esto ya lleva puesto en marcha desde el dos mil seis en otros países y fíjese si está contrastado y ahora

tenemos la evaluación de los demás países mire le voy a traer un estudio publicado en una de las más prestigiosas revistas de economía economics dos profesores en la universidad de milán

de los profesores que son muy complicados de leer señorías esto no es ninguna broma que han estudiado el impacto sobre la composición social del alumnado

se les llena la boca a ustedes con las reformas del pp el impacto social en el alumnado en las universidades de la introducción en italia

de ese sistema y según ese estudio lo que ha sucedido insisto en términos de composición social del alumnado es que

de los estudiantes con buenas notas en la educación secundaria que parten de situaciones socioeconómicas

es decir según la revista económica especializada en italia la implantación de este sistema ha producido un aumento de la equidad

y podríamos traer aquí estudios de francia de inglaterra de alemania

a las familias nada se abarata se posibilita que un señor

de los universitarios a la calle en españa sin ninguna titulación nosotros queremos que haya

el mayor porcentaje de oportunidades para todos aquellos que hoy

están tres años cuatro años dos años y medio pululando por la universidad y luego se van a su casa sin alcanzar ningún titulo títulos de tres años que les permitan entrar en el mercado laboral

universidad publica oportunidades de trabajo aquí y fuera en europa universidades

cambiar en españa reformar en españa la política la administración

reformar la universidad y la justicia es clave para que este país avance y la izquierda como usted está que dice que nos quedan dos telediario a ustedes no sé cuantos telediarios les quedan pero búsquese un sitio de esos sillones que son muy cómodos muy mullidos y que creo que tiene todo tipo de prebendas porque no sé si les quedan muchos más

muy buenas tardes en diferentes ocasiones hemos debatido en esta cámara acerca del retroceso que en los últimos tiempos están sufriendo

por parte de las decisiones o a consecuencia de las decisiones que últimamente está tomando el gobierno vasco

a las ayudas de la conciliación de la vida familiar lo que está provocando
que desde hace tres años las personas que se acogen a las isiltasuna mesedez decía que aquellas personas que se acogen a las ayudas

de una persona para el cuidado de menores o mayores

hasta el año siguiente las cifras son muy evidentes y hasta lo que nosotros hemos podido conocer

que se quedaron sin esa ayuda y en el año dos mil catorce

ya se ha anunciado que las solicitudes que se presenten este año dos mil quince aquellas que se presenten a partir

no podrán ser abonadas hasta el año dos mil dieciséis y cómo afecta esto a los ciudadanos

es la siguiente una familia con hijos o personas mayores a su cargo

o contratar a una persona de ayuda por cierto

son de mujeres para paliar la disminución económica que conlleva esta decisión se acogen a la ayuda establecida por el gobierno vasco y reconocida

y la respuesta que reciben por parte del gobierno es que efectivamente sí tienen derecho esa ayuda pero que como no hay una partida suficiente no podrán recibir ese dinero hasta el año siguiente por tanto

puede afrontar esta situación durante un año entero hasta recibir

como digo esta situación se viene produciendo que sepamos desde hace tres años y este último año dos mil quince pese a anunciarse

la aprobación del presupuesto y por el apoyo del partido socialista

de esa partida con la que se nos dijo que iba a ser suficiente para poder afrontar las solicitudes del año dos mil quince lo que nos anuncian es que solo va a haber

las solicitudes que haya hasta el mes de abril por que como hay pendientes

del año anterior pues el presupuesto se queda evidentemente corto las consecuencias de esta decisión

de un debate mantenido aquí en esta cámara las consecuencias es que tendrá un efecto disuasorio que se reducirá el número de solicitudes como ya estamos viendo que los datos están

y esto es por pura lógica señorías por tanto podemos calificar esta decisión del gobierno vasco esta decisión de no consignar un presupuesto suficiente de error un error que no podemos compartir desde luego desde el grupo popular no compartimos teniendo en cuenta además que la partida presupuestaria señorías y yo creo que esto es importante reflejarlo y explicarlo

ampliable esto qué quiere decir que aunque el gobierno establezca una partida x si es insuficiente

de aumentarla por tanto estamos ante una decisión voluntaria por parte de este gobierno de no afrontar la demanda de solicitudes que haya en materia de conciliación de la vida familiar y laboral

ninguna limitación legal que impida que el gobierno pueda tomar esta decisión

de que aquí lo que se está intentando es cuadrar el presupuesto del departamento con cargo a estas ayudas y nos parece además que es una decisión cicatera

además de estos recortes en las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral también se nos anuncio por parte del consejero

que las ayudas por hijo iban a sufrir también unos cambios el cambio era que en lugar de ser universal como hasta ahora

introducir un cambio de criterio y a partir de ahora esas ayudas se van a dar en función de la renta se nos explicó que esto era

pero vistos los números analizada la situación vemos que la situación es lo mismo es decir es llegar a un ahorro por parte del gobierno y creemos que es una decisión errónea e injusta

creemos que estas medidas tienen como objetivo un objetivo muy importante y más en el país vasco que es estimular la conciliación de la vida familiar y laboral y también el hecho de que somos

y que también nuestro número de habitantes no se ha visto modificado en los últimos años y cada vez va siendo una sociedad más envejecida por lo tanto es un problema como me han oído escuchar

que es un problema estructural es un problema que además hay que actuar en estos momentos para que las consecuencias las podamos ver en un futuro y podamos revertir

complicada es evidente que esta decisión tanto en cuanto a la conciliación de la vida familiar y laboral como a las ayudas por hijos es una decisión

y que beneficia al gobierno pero como les decía además les beneficia de una manera cicatera por que fíjense

y se encuentra con que el montante total de estas ayudas es de cincuenta y nueve millónes es decir que esto dentro de lo que es el conjunto del presupuesto de la comunidad autónoma vasca pues

y otra de las cosas que también nos ha llamado la atención es que a la hora de establecer este cambio de criterio en las ayudas por hijo que es pasar de que sean universales como recoge la ley

pasar a que sean en función de la renta se ha hecho de una manera que a nosotros también nos parece

no ha querido entrar en un debate y por tanto es lo que a nosotros nos hace pensar que lo que se ha buscado es un ajuste presupuestario y por qué lo digo porque miren el plan

es un plan que expira este año dos mil quince y yo creo que este tema merecía un debate en esta cámara precisamente

analizar cuáles son los resultados del plan que está en vigencia ahora ver exactamente cuál es la foto del año dos mil quince si han funcionado o no estas

si necesitan una revisión qué planteamiento hace el gobierno y poder debatir el siguiente plan me imagino que será a partir del dos mil dieciséis

decreto este gobierno ha tomado la decisión de modificar de forma unilateral esto que está recogido en la ley de apoyo a la familia porque la ley de apoyo a la familia como les digo

universalidad pero además también dice en su artículo diez punto cinco que

cada vez siendo ampliadas aumentadas precisamente para llegar a la convergencia con europa

del año dos mil veinte y eso es lo que a nosotros nos parece que es el camino que debemos seguir pero porque creo que además euskadi lo necesita tenemos que tomar ahora medidas como les digo

para revertir la situación en la que estamos y lo que estamos viendo es un gobierno que está tomando decisiones en la dirección contraria hacia atrás

si algo teníamos claro en esta cámara y en los consensos en las últimas legislaturas han sido evidentes en esta materia

teníamos claro que había un objetivo que compartíamos y que precisamente fue lo que se reflejó en esa ley de apoyo a la familia por tanto el partido popular ha presentado una

no de ley en la que rechazamos la decisión del gobierno porque la creemos errónea e injusta en la que pedimos que se deroguen esos decretos

plan que esperamos venga pronto y podamos debatir en esta cámara

se pueda seguir avanzando desde el punto de vista económico pero también con nuevas prestaciones con nuevas iniciativas en apoyo

familiar y laboral con nuevas iniciativas porque efectivamente muchas veces también se ha dicho aquí no solo es un aspecto económico

del apoyo a la familia y de la conciliación de la vida familiar y laboral por supuesto que hay otras medidas que son igual

probablemente si fuéramos entre todos capaces de implantarlas y hubiera más voluntad igual avanzaríamos mucho más en la conciliación de la vida familiar y laboral como es la adecuación de los horarios

están encima de la mesa pero creo que lo que no deberíamos hacer en ninguno de los casos es retroceder es retroceder por cuadrar un presupuesto insisto

en el marco de lo que es el presupuesto de la comunidad autónoma vasca veremos que en fin cincuenta y nueve millónes no es tanto como para tomar esa decisión que está teniendo consecuencias directas como les he explicado en la ciudadanía vasca

me parece que es suficientemente importante como para que este gobierno se plantee se replantee y rectifique esa decisión

y también las ayudas por hijo muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea

presidente andrea arratsalde on denoi decía ayer el consejero señor toña los efectos tan negativos que estaba teniendo la reforma laboral en la comunidad autónoma vasca no solamente no estaba generando

a la parte negativa en la dificultad de la conciliación de la vida laboral

ayer las familias en todas las modalidades cumplen funciones afectivas educativas

básicas e imprescindibles por eso es obligación de todo gobierno apoyar a las familias implementando reformas normativas y políticas concretas de actuación

en la conciliación de la vida familiar y laboral y en la natalidad promoviendo la extensión y la consolidación de recursos y servicios de apoyo

actuales y a los nuevos modelos familiares y por supuesto las ayudas económicas dirigidas a compensar los costes de conciliación de las familias que ven disminuidos sus ingresos por acogerse a excedencias o reducciones de jornada

desde el gobierno de españa ha hecho justo lo contrario ha sido el primero en perjudicar a las familias imponiendo el copago sanitario recortes en las becas la reforma laboral bajadas contratos precarios laminando la ley de la dependencia medidas todas ellas que están teniendo efectos muy negativos sobre las familias especialmente sobre las más vulnerables el pp no ha propiciado en absoluto ni la conciliación familiar y laboral ni el apoyo a las personas dependientes

y mucho menos el apoyo a las personas cuidadoras y a las familias

propiciado en absoluto políticas concretas de actuación diseñadas para avanzar en la corresponsabilidad y en la conciliación de la vida familiar y laboral y en la natalidad decía la señora quiroga que la gran mayoría de reducción de jornada

y yo pregunto por qué por qué son las mujeres las que piden la reducción de jornada

corresponsabilidad en los cuidados la sociedad vasca se encuentra inmersa en un proceso de envejecimiento poblacional derivado de un incremento

una de las más bajas de europa la edad de mancipación es cada vez más tardía

es más elevada y existen serias dificultades para conciliar la vida

señorías nos enfrentamos a nuevos retos que se deben de abordar desde las políticas públicas y esto no es baladí es evidente que se sigue primando la flexibilidad horaria en el mercado laboral la existencia de la brecha

el desigual reparto en las tareas del hogar y labores en el cuidado y para conseguir una conciliación real y efectiva es necesaria asumir y abordar

si miramos a europa se darán ustedes cuenta que los países que presentan menores tasas de desempleo femenino son aquellos que tienen más desarrolladas las políticas de corresponsabilidad

la ley de apoyo a las familias del dos mil ocho sienta las bases para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las familias prestando especial atención a las más vulnerables reconoce la importancia de la conciliación familiar y laboral y del fomento de acciones positivas en la corresponsabilidad de hombres y mujeres tanto en las tareas del hogar

sin embargo el gobierno vasco ha propiciado justo lo contrario es evidente el malestar que existe entre muchas personas que cumpliendo los requisitos no han podido cobrar las ayudas de conciliación

por agotamiento de crédito presupuestario y porque el gobierno vasco que presume de ser el gobierno de las personas no quiso ampliar una partida que es ampliable a sabiendas que esto laminaba el objetivo de esas ayudas que es compensar económicamente

es evidente que el gobierno vasco ha hecho caso omiso de los acuerdos de este parlamento el gobierno vasco

ha hecho caso omiso de la petición de representantes de la plataforma afectadas por el impago de las ayudas para la conciliación familiar y laboral que comparecieron también en este parlamento el veintidós de diciembre pasado y el gobierno vasco ha hecho caso omiso de la resolución del ararteko de diciembre de dos mil catorce que recomienda al gobierno vasco mantener

a la conciliación familiar y laboral y tratar de aumentarlas en el futuro que las políticas de apoyo a las familias previstas a futuro se diseñen con estándares europeos

que no considera adecuada la tramitación de la modificación de los decretos recientemente aprobados por el gobierno vasco relativo a las ayudas económicas

a la conciliación de la vida familiar o laboral dado que plantean en su conjunto modificaciones

el ces considera pertinente un debate más profundo sobre estos cambios con la sociedad civil agentes sociales a partir de una propuesta integrada y transparente del ejecutivo cuestión que no se ha dado

aunque se mantienen como derechos subjetivos se condicionan ahora unos requisitos económicos que suponen un retroceso en la convergencia con la unión europea dos mil veinte

en la memoria económica la práctica del ajuste de gasto que se anuncia viene a dar continuidad

al menos en este último año los socialistas vascos mostramos nuestro desacuerdo con los recortes en las ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar en el pleno de octubre de dos mil catorce

a la conciliación a todas las personas que cumplían con los requisitos así como

pase de diecisiete coma tres millónes a treinta y uno coma siete millónes de euros aun así tal y como ha reconocido

para abonar las cantidades pendientes del dos mil catorce y todas las del dos mil quince recientemente el dieciséis de marzo debatimos

a instancia del grupo socialista y acordamos pedir de nuevo al gobierno la inmediata habilitación de la partida económica para hacer frente al pago de ayudas a la conciliación de la vida

la total satisfacción de las solicitudes de ayuda del dos mil quince siempre que estas cumplan los requisitos hoy debatimos de nuevo en este parlamento una pnl sobre los recortes

de la vida familiar y laboral y los socialistas hemos querido plasmar en nuestra enmienda tres cuestiones importantes primero es imprescindible que se realice un informe que refleje primero esa situación actual de la configuración de las familias en la comunidad autónoma detallando niveles de renta

así como una relación de recursos servicios y medidas económicas de apoyo a las familias vascas existentes en todos los ámbitos laboral fiscal educativo sanitario

de la aplicación de las medidas contempladas en ese tres plan interinstitucional de apoyo a las familias dos mil catorce dos mil quince la incidencia que han tenido en el fomento de la natalidad y las posibilidades de actuación para mejorar el sistema de protección existente y avanzar hacia niveles de la

esto es importantísimo y esto el gobierno vasco al menos

en segundo lugar entendemos que este gobierno debe avanzar en la corresponsabilidad en los cuidados familiares y promover la extensión y consolidación de recursos y servicios

dirigidas a compensar los costes de conciliación de las familias que ven disminuidos sus ingresos por acogerse a medidas de conciliación de la vida

de la ley trece barra dos mil ocho de apoyo a las familias incorporando criterios que permitan un reparto más justo avanzando hacia estándares europeos y en tercer lugar

que hagan posible una conciliación real y eficaz entre la vida laboral y las obligaciones de cuidado a la infancia a las personas mayores

o en situación también de extrema gravedad diseñando una hoja de ruta para alcanzar el nivel de las políticas públicas europeas que evidentemente también pedimos se presenten en este parlamento ante la comisión de empleo y políticas sociales antes de finalizar este año dos mil quince ofreciendo recursos presupuestarios servicios y ayudas públicas

han sido recogidas en la enmienda de transacción que finalmente hemos firmado con el grupo eh bildu tenemos que mostrar satisfacción por este acuerdo alcanzado y entendemos que es necesario porque el gobierno vasco ha incumplido reiteradamente su palabra

de este parlamento y de las peticiones que propiamente aquí se han acordado y por supuesto a las demandas de la sociedad civil y de los agentes sociales que se han mostrado especialmente críticos con el impago de las ayudas en el dos mil catorce y con la tramitación de los nuevos decretos de modificación

por hijo hijas y con el decreto de ayudas a la conciliación

muchas de las cosas que se han dicho por parte de los dos grupos intervinientes en el debate de hoy se han dicho cosas interesantes que efectivamente upyd también comparte pero quiero explicar muy sucintamente las razones por las que vamos a votar en contra de la iniciativa planteada por el grupo popular

nuestra enmienda lo cierto es que el grupo popular lo que viene

de la iniciativa planteada por el grupo popular más allá de criticar

a los recortes impulsados por este gobierno compartimos con el partido popular y con el resto de grupos

de estos recortes impulsados por este gobierno porque efectivamente recortes los ha habido y son evidentes y se han denunciado en ocasiones anteriores por parte de este parlamento y se han producido nuevos recortes en la aprobación de este último decreto que este gobierno aprobado se han producido recortes como luego demostraré si atendemos a los datos concretos por lo tanto por esto básicamente votamos en contra de la iniciativa del grupo popular nosotros pensamos que sí hay que tener en cuenta el nivel de renta de los posibles beneficiarios hay que tener en cuenta a la hora de conceder ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar y a la hora de conceder ayudas por hijos hay que tener en cuenta esto es una política progresista y evidentemente compartimos esa idea por eso vamos a votar de la iniciativa planteada por el pp más allá de que compartimos el punto tres de esta iniciativa por lo tanto vamos a votar

enmienda qué es lo que dice nuestra enmienda pues planteamos

retrasos incluidos que tenemos o que hemos venido denunciando

en este parlamento e instamos al gobierno a modificar el decreto de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo y el decreto por el que se modifican las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral para que manteniendo el criterio de aplicación de los niveles de renta familiar

se amplíen dichas ayudas a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos para los que fueron diseñadas así como de que todas las personas que cumplan los requisitos establecidos

es que el gobierno con la excusa de que introduce una mayor progresividad con esa excusa lo que plantee despuéssea recortes en las ayudas como efectivamente se propone y se ha hecho y

en la que se integren las ayudas a la conciliación a la dependencia las ayudas por hijo o hija a cargo así como cualquier otra medida que sea necesaria para favorecer este proceso de adaptación y renovación dicha estrategia debe tener en cuenta su inserción en el marco nacional e internacional si atendemos

al modelo o si comparamos el modelo que teníamos antes con lo que se propone ahora por parte de este gobierno concluimos claramente que ha habido recorte como supongo el grupo nacionalistas vascos y el propio consejero podrán reconocer sin ningún tipo de problema en lo que se refiere a las ayudas por hijos

se mantiene como estaba hasta ahora no ha habido cambio sin embargo en lo que se refiere al segundo

se incrementan las ayudas para aquellas personas aquellas familias con ingresos inferiores euros se produce un incremento aunque un incremento leve en lo que se refiere a las familias o a los beneficiarios con rentas superiores a veinte mil euros y en lo que se refiere a los beneficiarios

se produce una reducción y evidentemente nosotros no pensamos que haya que reducir las ayudas por hijos a unos beneficiarios que obtienen unas rentas anuales

injusta por lo tanto se podría haber introducido progresividad

implicara recortes para determinados colectivos y en lo que se refiere a las ayudas por tercer hijo pues cosa parecida en lo que se refiere a los beneficiarios

no hay diferencia aquí tampoco hay diferencia no se produce ningún tipo de incremento sin embargo

y para los beneficiarios con rentas superiores a treinta mil euros

una reducción evidente por lo tanto el dibujo global es que efectivamente se están produciendo recortes aunque las políticas de incentivo de la natalidad deben estar dirigidas a todos los colectivos

las ayudas económicas por hijo deben dirigirse en nuestra opinión preferentemente a las rentas más bajas ya que aunque pueden existir desincentivos a tener un hijo en todos los estratos de renta aquellos impedimentos relacionados con la situación económica de las familias afectan especialmente como es obvio a las rentas más bajas

pero las ayudas económicas deben estar dirigidas especialmente a las personas con rentas

que nosotros hacemos apuntamos como modificaciones positivas

se dupliquen si quien origina la ayuda económica tiene reconocida una discapacidad de porcentaje igual o superior al treinta y tres por ciento o una situación de dependencia reconocida

que posibilita el acceso a una ayuda económica por reducción esto sí nos parece correcto esto que ha apuntado sí nos parece

es positivo que las ayudas se orienten en función de la renta y que se amplíen los periodos así como que se dupliquen las ayudas en situaciones de discapacidad sin embargo nos parece

inaceptable que las ayudas que por un lado se incrementan por otro se reduzcan sustancialmente especialmente como he dicho en el caso de las ayudas por segundo hijo y tercer

del mismo modo que debería procederse a una diferenciación mayor porque obviamente no es lo mismo cobrar veinte mil que treinta mil y no digamos ya treinta mil uno euros que por lo tanto también llamaríamos a una mayor progresividad en fin

nosotros mantenemos nuestra enmienda y vamos a votar a favor de nuestra enmienda que se tenga en cuenta la renta nos parece bien que se aprovechen estos cambios introducidos

para introducir a continuación recortes nos parece mal

los recortes impulsados en esta materia por parte del gobierno vasco por eso no compartimos por eso no compartimos la iniciativa planteada por el grupo popular

firmada entre eh bildu y grupo socialista tengo que decir que el grupo socialista no ha intentado llegar a ningún tipo de transaccional con upyd

tienen los votos suficientes para que su iniciativa salga aprobada

pueden haberse visto desincentivadas al pensar que el hecho de haberse agotado el crédito significaba que no se iban a pagar más ayudas eta hau benetan

esaten zuen resulta curioso que se diga que se han hecho recortes porque para la administración el efecto de estos cambios

no hemos bajado nada del presupuesto las ayudas eta ez da egia

haremos una breve referencia a los distintos debates tenidos al respecto porque a nuestro juicio están relacionaos todos ellos y también otro representantes que me han

es cierto que se produjo un retraso en el abono de las solicitudes de ayuda por conciliación del año dos mil catorce

insisto un retraso que se ha pretendido subsanar incrementando la partida destinada a este fin en los presupuestos del año en curso de diecisiete millónes de euros en dos mil catorce

dentro del plazo establecido en la normativa que la regula por varios motivos principalmente uno

anterior dos porque como todos ustedes conocen las previsiones económicas permiten mirar con algo más de optimismo al futuro y el departamento

en el bienestar de las personas y tres porque las personas todas las personas

como hemos dicho en varias ocasiones el departamento dirigido por el con el consejero toña está inmerso en una reflexión profunda

a conciliar la vida familiar y laboral que no solo se puede centrar en la prestación de ayudas económicas a nuestro juicio para ello se están examinando también

para en la medida de lo posible acercarnos a aquellas que mayor y mejor protección otorgan a las mismas

negamos la mayor señora quiroga no ha habido a pesar de que lo repiten hasta la saciedad y es incierto que no se mantenga su carácter universal antes de explicar la modificación pretendida por el gobierno recordarle

incluso con mayoría absoluta no tienen ninguna medida de apoyo a la conciliación laboral y familiar comparable a la que existe en euskadi ustedes faltan a la verdad cuando manifiestan que el gobierno pretende quitar el carácter universal a estas ayudas el gobierno

lo que pretende es un reparto más justo equitativo

maneiro también ha hablado en este sentido ayudar más a los que más tienen

le parece mal realizar un reparto más justo solidario y equitativo de las ayudas de la conciliación de la vida familiar y laboral

decía que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizarlas y mejorarlas siempre actuando en beneficio de las personas que de verdad

que requiere de un apoyo inmediato pues eso es precisamente lo que quiere hacer el gobierno con la modificación del decreto de las ayudas de conciliación ayudar y apoyar más a los que más lo necesitan si lo dice el partido popular está bien y si lo pone en práctica el gobierno vasco está mal señora quiroga

ez diela ahalmen ekonomiko bera ematen osaketa ezberdineko familia unitateei es evidente que en términos de poder adquisitivo y de nivel de vida

a unidades familiares con diferente composición por eso entendemos que es importante aplicar la renta familiar estandarizada a todas las líneas de apoyo económico a las familias es una medida de justicia que ha sido reclamada por varias organizaciones de familias

habida cuenta que la medida adoptada por el gobierno pretende una mayor cohesión social no apoyaremos el segundo punto de la iniciativa original ni el primero de la iniciativa original de eh bildu que

respecto al tercero hemos dejado meridianamente claro que el gobierno está realizando un examen profundo de la situación actual

impulsar y que será evidentemente debidamente presentada una vez consensuada con expertos y otras instituciones

eta zuok kontra intentan vender que todo lo que hace

en este caso la política familiar pero me gustaría que explicaran por qué les parece que no debe aplicarse la renta familiar estandarizada a las ayudas a la conciliación

es dar más a los que menos tienen una forma de conseguir una sociedad más cohesionada y justa besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea

gracias señora presidenta no está el señor egibar

que las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral se van a pagar en este año a mí me parece que debemos ser mucho más serios en estos debates sobre todo porque

en esta posición por qué porque los argumentos que usted ha utilizado aquí son además argumentos que ni siquiera se ajustan a la verdad porque nos ha hablado que ha habido unos retrasos en el año dos mil catorce no es verdad porque la carta que se les ha enviado

no les dicen que hay un retraso sino que no se les va a poder abonar en ese año la ayuda porque no hay presupuesto

el dos mil catorce son dieciséis mil las que se han quedado sin ayuda en el año dos mil trece fueron por eso se va acumulando un retraso que hace que ese presupuesto es evidentemente insuficiente

a las solicitudes y dicho esto me van a permitir un minuto de desahogo por qué digo esto porque escuchando a la señora sarasua

y tan indignada porque el dinero de la ayuda a la conciliación familiar y laboral no llega

del gobierno vasco nos podríamos evitar esta situación si ustedes hubieran apoyado la reforma de la ley

y hubieran convertido estas ayudas en un derecho subjetivo es una pena que no se hubiera hecho y que no hubiéramos podido tener ni siquiera

posibilidad de debatir porque todas ustedes utilizaron el turno de explicación de voto menos el señor maneiro por eso decía todas pero

no estaríamos en este momento debatiendo sobre esto porque lo hubiéramos garantizado igual que las ayudas por hijos son un derecho subjetivo y como tal es universal y si se quiere modificar eso

está en su derecho usted o el grupo que apoya al gobierno o el propio gobierno a traer una modificación

lo que deberían hacer es modificar la ley no vía decreto fundamentalmente lo hacen así porque no tienen mayoría en esta cámara y no quieren someterse a ese debate

pero todo esto señorías es que estamos hablando de unas cantidades que es que estamos hablando de unas cantidades cuánto se puede estar ahorrando realmente

ajustando el presupuesto del departamento afectando a una política que sí que es verdad quehabrá que ampliarla que

pero que esta es una que existía y que tenía un coste que tampoco es algo en fin descuadre el presupuesto del departamento

lo que ocurre es que hay una voluntad que no la puedo entender yo a estas alturas créanme

y todavía no soy capaz de entendercómo se ha tomado una decisión tan injusta tan cicatera y permítame también tan torpe respecto

y usted si quiere me pone en comparación con el resto de las comunidades autónomas me pone en comparación con quien quiera pero la realidad es que ustedes han tomado una decisión que hoy por hoy no se comprende y estamos hablando de la conciliación de la vida familiar y laboral y la señora sarasua me dice por qué no son todas mujeres como si yo tuviera la culpa de que fueran todas mujeres no es que es una realidad hoy por hoy año dos mil quince son las mujeres en su mayoría las que tienen que renunciar a su carrera profesional para dedicarse al cuidado de los hijos nos gusta no nos gustaría cambiarlo sí

a las mujeres o no lo va a cambiar nadie y si no lo convertimos en un derecho subjetivo como trajimos aquí esa iniciativa vemos que estamos

que se ven en la necesidad o no no lo sé de tener que reducir la jornada o una excedencia o tener que contratar a una persona

porque desde esta administración no se le garantiza que al menos reciban esa ayuda por eso me da pena que

de las posiciones partidistas pues prefieran venir aquí a echar en cara al partido popular la reforma laboral los recortes en no sé que

porque mientras tanto lo que va a ocurrir es que esto sigue sin solucionarse y mucho más cuando además ustedes son los que han permitido que se apruebe ese presupuesto

como creo que no estaría haciendo no sería coherente con lo que estoy diciendo aquí

echar más leña al fuego sobre las posiciones que hemos mantenido últimamente y me quedo con el acuerdo que efectivamente el partido popular va a apoyar esa enmienda de transacción

que nos hubiera gustado que en una situación de normalidad absoluta haber firmado ojalá algún día eso pueda ocurrir
amaitzen joan mientras tanto me quedo con la decisión gracias señora presidenta enseguida acabo con la decisión mayoritaria de esta cámara de rechazar una medida que nos parece injusta y cicatera muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea euskal sozialistak taldeko

señora quiroga usted entiendo que nos echa la culpa de que todo lo que pasa es por que el partido socialista no apoyó una proposición que ustedes hicieron para convertir las ayudas en un derecho subjetivo

una cosa es conciliar y otra cosa es la corresponsabilidad son dos palabras diferentes y

nosotros entendemos que la igualdad y la corresponsabilidad es fundamental en los cuidados porque es bueno además para las familias

en las políticas públicas de apoyo a la conciliación laboral y familiar y contribuir a la corresponsabilidad y evidentemente la reforma laboral ha sido negativa porque nos ha perjudicado sobremanera a las mujeres que existe una brecha salarial

y muchas veces en las decisiones influyen también las condiciones

en la dependencia en el tema de la salud en los campos de las políticas sociales

de aquello estamos aquí y ustedes no apoyaron una modificación que planteó el partido socialistas para que en el decreto de las aes en tanto en cuanto se diera la situación de crisis sería obligatorio cubrir todas las ayudas entonces cada uno tiene sus posiciones nosotros lo que seguimos es defendiendo lo mismo de todas maneras yo me he molestado en revisar los programas electorales de todos los partidos

hablan de la crisis económica que está provocando que sacar adelante a la familia hoy en día requiere grandes esfuerzos que el desempleo se ha metido de lleno en los

y el agua en cuanto al apoyo activo de las familias hablan de la especial consideración a las familias numerosas y familias

aquí hablan de fortalecer los sistemas de coordinación entre las administraciones públicas y organizaciones sociales en la asistencia a las personas y a las familias que están sobre todo en riesgo de exclusión social y pobreza sobrevenida y aquí hablan de la protección a la maternidad de la nacionalización y flexibilización de los horarios del trabajo en las

revalorización automática del ipc en cada ejercicio de las ayudas con hijos etcétera yo en este programa no les oigo hablar en ningún momento

de la vida laboral y familiar y me lo he leído entero se lo aseguro en cuanto al partido nacionalista vasco lo que está pasando está pasando y sino

de personas afectadas por los impagos de las ayudas a la conciliación

y bueno sí ustedes están inmersos en una reflexión profunda y dura y dura y dura y dura esa reflexión profunda para cuando va a venir creo que el problema está ya es que ya estaba el año pasado ya estaba en el dos mil trece por lo tanto llevan ustedes ya un tiempo de legislatura y yo creo que hay que hablar

la política por la que apuesta el gobierno de las personas y el gobierno nacionalista vasco miren esto es una resolución que me ha enviado una persona y unas cuantas más

el veintinueve de julio del dos mil catorce ya pone resolución favorable la orden de pago

son dos órdenes de pago ha pagado doblemente el dieciocho de marzo de este año y el veinticinco de marzo de este año y luego encima han recibido una carta exigiéndoles

y a día de hoy se están pagando las ayudas de abril todo esto está contado

que trabaja que quiere conciliar pero que está fastidiada

si ustedes se han preguntado quiénes son las familias que están recibiendo las ayudas

esas familias que se van a quedar dentro o fuera con el nuevo decreto yo tengo la respuesta pero me gustaría que me lo contestase la portavoz del partido nacionalista vasco

están afectando a las personas y que esas personas a las que le están afectando no pueden venir aquí a esta cámara pero sí vienen a las comisiones y cuentan

entiendo que ustedes les habrán escuchado igual que nosotros por lo tanto

en la radio que eso se va a pagar sí sí el se ha comprometido pero veremos a ver si es una palabra del señor egibar

que reflexione y que entienda que las políticas de conciliación son importantes pero también las políticas públicas para poder lograr el incremento en la natalidad que es un problema que tenemos

por lo tanto hagan esa reflexión y si ustedes se han equivocado

restantes grupos de la oposición y votaré a favor de la transaccional gracias eskerrik asko maneiro jauna arrondo andrea zurea da hitza

con la modificación de los decretos es conseguir un sistema más justo y solidario que consigue una mayor cohesión y que redunda en beneficio de toda la sociedad conseguir una distribución más justa solidaria y equitativa de las ayudas a la conciliación mal dar más a los que menos tienen también les parece mal porque no me han contestado a ninguna de las preguntas que les he hecho en la primera intervención

las personas que solicitan las ayudas a la conciliación normalmente tienen unos ingresos medios o altos se quedan fuera las personas que menos tienen y por esto también
creíamos que era necesaria la modificación de los decretos isiltasuna mesedez

a aquellas personas que su situación económica sí les puede condicionar no tanto el tener un primer hijo pero sí el segundo o sucesivos

o excedencia respecto al tema y pequeño debate que han tenido entre el partido socialista y el partido popular referente a por qué

son solicitadas por mujeres recordarles que el gobierno ibarretxe puso en marcha una medida de discriminación positiva que lo que hacía era abonar mayor cantidad

solicitudes de reducción o excedencia las hacían

y el gobierno socialista de patxi lópez con la inestimable

dejaron sin efecto estas ayudas al partido socialista decirle señora sarasua hombre

de poner más dinero para esta partida le recuerdo

con el partido nacionalista vasco para este año dos mil quince entonces es un poco cuando menos incongruente que nos esté pidiendo eso en este momento ya ha hecho referencia el dos mil catorce pero es que en el dos mil catorce ya estábamos con el presupuesto del dos mil catorce que ustedes no habían aprobado pero este del quince sí por lo tanto que nos estén pidiendo ahora en mayo en casi mayo en abril

en un debate anterior usted defendió que los decretos

y exclusiva competencia del ejecutivo por lo tanto la verdad que no entiendo que ahora nos venga aquí

y que van a apoyar el resto de los partidos de la oposición a pedir su rechazo y reelaboración

no lo entiendo muy bien y después ha dedicado parte importante de su intervención

a la totalidad que después ha sido modificada por la transaccional y hablaba y son sus palabras de aspectos muy importantes y leía lo que habían reflejado en su enmienda a la totalidad detallando nivel de renta integrantes de la unidad familiar número de hijos e hijas

nada de esto que tan importante le parecía según lo que

en la enmienda transaccional y además todavía nos sorprende más porque usted sabe y lo habíamos comunicado públicamente

en su totalidad ese punto de su enmienda a la totalidad por lo tanto no entendemos que si tan importante era no lo haya recogido en la transaccional cuando

parte tan importante de su enmienda la señora quiroga

habíamos hecho que el gobierno había hecho una modificación vía decreto porque no tenía la mayoría

que usted señora quiroga representante del partido popular me hable de los decretos a los que tan acostumbrados nos tiene todos los viernes el señor mariano rajoy los decretazos que casi hasta usted se le escapa la palabra el decretazo
cuando además tiene mayoría absoluta no creo que sea un problema de mayoría isiltasuna

porque cree que es la forma más justa y solidaria de repartir las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral

eso ya es problema de ustedes de eh bildu del pp pero la verdad que no entendemos nos parece un simple paripé el que no se firme una

de sus puntos de la iniciativa original por lo tanto desde luego no nos parece un ejercicio por lo menos de transparencia respecto al resto de grupos ni nada un auténtico paripé y que lo único que busca es supongo que réditos antes sus electores en esta como decía antes en este período de pre campaña

baitie consideramos que la memoria el reconocimiento y la justicia son fundamentos vitales para construir progresivamente la convivencia futura entre estos dos pueblos por lo que entendemos que una reconciliación durable comporta

creemos por consiguiente necesaria la existencia de un diálogo diáfano y sincero

para edificar un futuro común que permita cerrar definitiva y sanamente este trágico capítulo de la historia en este sentido abogamos para que este centenario constituya un catalizador para el reinicio de los llamados protocolos de zúrich inaugurados en el dos mil nueve que constituyeron

las relaciones diplomáticas entre las dos naciones y que se frustró un año más tarde por las visiones dispares de sus relaciones históricas eusko legebiltzarrak uste du